quisiera remarcar antes la cámara que para el departamento de salud

trabajar coordinadamente con asuntos sociales tal como expusimos el pasado dieciocho de febrero en la comisión de salud y consumo

a la cronicidad la vejez y la dependencia para ello queremos abrir una etapa

entre los departamentos de salud y el departamento de acción social vivienda y empleo del gobierno vasco con las demás instituciones implicadas para coordinar nuestra interdependencia en la prestación de un servicio de calidad en este planteamiento de trabajo coordinado no estamos pensando solo en las personas mayores en situación de dependencia

en personas de cualquier edad con cualquier discapacidad incluido los colectivos con riesgo o en riesgo de exclusión

documento marco ampliamente consensuado entre el gobierno vasco las diputaciones forales y la asociación de municipios vascos eudel para conseguir interacciones efectivas estamos convencidos de que se deben desarrollar actuaciones concertadas

basadas en los siguientes ejes de actuación primero elaboraremos un plan conjunto de acción sociosanitaria que defina metas

dentro de una visión compartida entre todas las instituciones implicadas en el marco de este plan orientaremos la atención sociosanitaria hacia la prevención analizaremos las necesidades prioritarias de intervención implementaremos

además de considerar el decreto de atención temprana emanado del consejo vasco de atención sociosanitaria

plantearemos la colaboración entre los profesionales de ambos sectores para ello elaboraremos un plan de comunicación sociosanitaria

sociosanitaria entendemos que el domicilio es el lugar más adecuado para recibir la atención para ello desplegaremos el modelo de atención desde el domicilio hasta dispositivos más complejos si es que fueran necesarios trabajaremos en la definición

la desinstitucionalización de las personas el tercer eje de colaboración se basará en la elaboración de un sistema de información único y compartido para ello queremos diseñar un sistema que compatibilice los actuales sistemas de información de historia clínica sanitaria

osabide con los sistemas de información de servicios sociales para conseguir un uso común finalmente

a la mejora del modelo de prestación farmacéutica en los centros sociales todas estas acciones

se pondrán en marcha partiendo la implementación de una fórmula de gobierno integradora a través del consejo vasco de atención sociosanitaria de los consejos territoriales que de él emanan y de la comisión de coordinación permanente para finalizar

de coordinación sanitaria operativa capaz de impulsar todas las líneas estratégicas

una vez condenado protagonizó varios intentos de evasión fugándose incluso a paraguay lo que muestra la amplia red de apoyos y conexiones policiales con que contaba y de las que disfrutaba el miembro del batallón vasco español según se ha podido conocer por recientes informaciones periodísticas el actual

en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático por mediación de

no es el primer caso de convictos por delitos de terrorismo de estado ejecuciones extrajudiciales o incluso tortura que son inmediatamente reintegrados

entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a quien hellín ofertaba servicios se encuentra la ertzaintza qué información tiene al respecto la consejera de seguridad

legebiltzarkideok efectivamente me pregunta usted por una información aparecida en el periódico en el que hace referencia a una contratación

de una persona que ha resultado ser un convicto yo tengo que decirle que según consta en el departamento de seguridad antes de interior

ninguna relación contractual ni con la empresa a la que hace referencia la información periodística ni con

o el especialista al que hace mención en su pregunta pero tengo que aclararle

en el departamento hemos visto que en el año dos mil ocho en la sección de nuevas tecnologías de la unidad de policía

se solicitó una formación sobre una cuestión técnica de su competencia como era la obtención y análisis de datos almacenados en dispositivos de telefonía

nuevas tecnologías realizó la búsqueda de los centros formativos que podrían impartir este tipo de formación y dieron con la empresa

cursos que se impartieron en madrid en noviembre de dos mil ocho y después de constatar que se habían impartido este tipo de actividades formativas a otras policías estatales

la jefatura de unidad de policía científica aprobó la propuesta

y cuatro agentes participaron en un curso de cuarenta y cinco horas impartido en madrid por la empresa new technology perteneciente a la sociedad mercantil computer store es verdad que después en el material didáctico que facilitó la empresa organizadora del curso al menos uno de los instructores que impartió la materia fue

llamar en aquel entonces posteriormente y ahora a raíz de las informaciones periodísticas hemos sabido que no es otro que emilio hellín efectivamente la persona que fue condenada

telefonía móvil y obtención de evidencias digitales para cuerpos policiales eta euren artean dirección general de guardia civil grupos especialistas de la guardia civil ministerio de defensa cuerpo nacional de policía policía autonómica española

a dar explicaciones sobre este tema anunciar investigaciones internas o a considerar al menos los datos que estaban sobre la mesa no comprendemos que la ertzaintza

en este tipo de cursos de formación sin realizar la más mínima investigación previa de quién los está impartiendo no comprendemos

si no es por la presentación de esta pregunta por este grupo parlamentario en cualquier caso consideramos que es una negligencia grave de su departamento

no aclarar estos términos y una falta total de sensibilidad hacia la angustia y el dolor que la familia ha expresado públicamente al conocer

continúa en labores de asesoría policial manteníamos esta pregunta porque conocíamos los indicios de la relación

pero es que además no cejaremos en el empeño hasta conocer quiénes son los mentores y las conexiones que una persona como esta tiene todavía hoy en día dentro
de los estamentos policiales besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

y puedo compartir con usted cualquier objeción ética a este tipo de situaciones pero también le puedo decir que la ertzaintza no establece ni realiza la ficha policial ni de los instructores de los cursos ni de los compañeros que asisten

dicho esto insisto por parte del departamento de seguridad antes de interior existe ni ha existido ninguna relación contractual ni con la empresa ni con la persona en cuestión son una serie de agentes cuatro agentes que asisten a un curso un curso que después de valorarlo desde el punto de vista

interesante para la formación de los agentes se autoriza y los cuatro agentes asisten a un curso de cuarenta y cinco horas curso que posteriormente

a este curso dicho esto no tengo nada más que añadir muchas gracias

reyes jauna zurea da hitza bai presidente andrea doy con su permiso por formulada la pregunta

el gobierno está trabajando en este momento en poner en marcha un programa público de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas autónomos

así como para la adecuación del crédito a corto plazo y para la refinanciación de operaciones de corto plazo para poderlas pasar a medio plazo la financiación en este momento en las

yo mismo con diferentes agentes económicos y sociales como pueden ser entidades de previsión social voluntaria entidades financieras

en un marco de colaboración multilateral y próximamente como anunció el lehendakari hace unos días durante el primer trimestre del año

el programa público de apoyo financiero a la financiación estará aprobado

las pequeñas y medianas empresas autónomos y profesionales puedan disponer de este marco de apoyo financiero que en este momento es tan necesario en la medida en que proyectos económicos y de empresas que son viables están siendo afectados por la falta de financiación en el mercado

iba dirigida la pregunta al lehendakari es cierto que las pymes necesitan ayuda estamos tan de acuerdo que durante la pasada legislatura se aplicaron diversos programas para ayudar

a reavales y en cierto modo ha admitido esa continuidad en el trabajo porque todos sabemos que mantener la actividad empresarial es mantener el empleo

el año pasado concretamente el gobierno socialista proyectó un programa extraordinario para la financiación de las empresas que con una dotación de mil millónes moviliza

millónes y precisamente una de las actuaciones más novedosas de ese programa

a través de las entidades financieras dotado con cuatrocientos millónes de euros lo que supone movilizar prestamos por valor de seiscientos sesenta y seis millónes y todo ello con acuerdo sí con las entidades financieras como no podía ser de otra manera firmado la cuestión es que si este programa está vivo y cubre una cantidad equivalente a la que está barajando usted

por qué no lo impulsa lo publicita lo incentiva con las empresas en vez de definir uno nuevo al que se ha referido que tiene tantos problemas y le voy a decir hoy

que dos problemas muy importantes uno está relacionado con la procedencia del capital

de las epsv que es un capital de los trabajadores pero sin que las juntas de gobierno

tendrán ustedes encuentros multilaterales están hablando desde diciembre constantemente en la prensa

de que los sindicatos que tienen el cincuenta por ciento del voto en las juntas de gobierno de esas entidades de empleo han rechazado públicamente el apoyo a este plan

para las pensiones un segundo problema es que

del valor de los prestamos han tenido en cuenta que eso puede vulnerar la normativa europea que puede constituirse como ayudas de estado

es una de las cuestiones que bruselas pone siempre sobre la mesa

estas operaciones en cualquier caso quiero recordarle que el banco europeo de inversiones ha puesto ya

una línea de crédito de doscientos millónes de euros que con lo que aportan las entidades financieras son cuatrocientos prácticamente lo que están manejando y lo tienen ahí úsenlo

a lo que pasó hace veinte años con las vacaciones fiscales que todavía está coleando por una ocurrencia del pnv por cierto úsenlo da la impresión

también porque hay fondos del ico disponibles a partir de fondos del banco europeo de inversiones

ha adoptado una decisión a petición de confebask que tiene

cómo salir de este embrollo debería creo que debería estarse ocupándose de potenciar lo que ya funciona aunque lo hayan hecho los socialistas porque el desempleo
es una tragedia muy real no un juego político gracias eskerrik asko reyes jauna amaitzeko jaurlaritzaren

señor reyes el gobierno tiene un programa de apoyo financiero propio le quiero decir

poner en marcha algo que tuvo un éxito tremendo cuando

que supuso la movilización con recursos propios del gobierno de cuatrocientos ochenta y cinco millónes de euros programa que luego ustedes continuaron a lo largo de la legislatura hasta mediados del año dos mil doce

no de inyección de fondos sino únicamente de utilizar la cláusula de garantías que ya la ley de presupuestos contenía a efectos de realizar avales directos o de reafianzamiento pero no de inyección de fondos lo que es simplemente realizar avales directamente por el gobierno segundo lugar decirle

primero con un criterio de autonomía de libre disposición

y rentabilidad entienda oportuno que sus inversiones en vez de ir a la deuda del tesoro

podrá intervenir aquí nadie va a imponer nada el gobierno no es nadie para forzar

tercer lugar le digo también que las entidades financieras podrán participar voluntariamente también estamos trabajando en suscribir dentro del programa marco del decreto un convenio

actuando con recursos propios o con recursos que como es habitual las entidades financieras captan en el mercado y también le tengo que decir que esta es una iniciativa del gobierno otros agentes económicos como usted ha mencionado o alguna organización empresarial

se aprobará antes de finalizar el primer trimestre del año

hay en la ley de presupuestos actualmente prorrogada una garantía para hacer avales pero no de inyección directa nosotros lo que pretendemos y por eso estamos funcionando con la prórroga le digo

durante los años dos mil nueve a dos mil once fueron

y treinta y uno el dos mil once el problema de los avales directos o reafianzados sesenta cuarenta tiene el problema de la centrifugación de créditos

y en este momento estamos analizando los riegos que eso puede suponer para el costo de la administración pública

andrea lehendakari jauna en los últimos tiempos usted y su

importantes que encima nos avisan de que la tijera va a ser notable en los próximos presupuestos

actuación no cuadra con las criticas que desde sus filas se realizan a los ajustes que está teniendo que hacer el gobierno de españa de hecho

una enmienda en este parlamento en la que decía que el parlamento vasco reitera su rechazo a los recortes laborales y sociales del gobierno

quiero que me responda a qué diferencias sustanciales existen entre los ajustes de la administración general del estado y los ajustes de la administración autonómica del país vasco que usted propone es decir que me diga que por qué

señor basagoiti usted conoce bien la realidad presupuestaria de la administración general del estado y también la realidad presupuestaria de la administración pública vasca usted sabe que este gobierno está realizando un ejercicio de realismo presupuestario que no se había realizado con anterioridad

este ejercicio supone asumir con responsabilidad la cuenta de ingresos y de gastos lo hemos hecho sabiendo los datos

y en el consejo vasco de finanzas alcanzando un acuerdo compartido para marcar la disponibilidad de ingresos disponibles para el año dos mil trece y lo hemos hecho en la aceptación

para el presente año una cifra que no hemos elegido nosotras y nosotros pero que en ningún caso vamos a superar se lo aseguro usted ha conocido y es responsable también señor basagoiti de presupuestos con un déficit de partida más elevado

siendo cubierto a través del endeudamiento y con ingresos extraordinarios imprevistos y esto ahora no va a suceder esto es afrontar la situación con realismo

la diferencia está en la asunción desde el día veintitrés de octubre del año pasado veintitrés de octubre del año pasado dos días más tarde de celebradas las elecciones autonómicas

desde el veintitrés de octubre del año pasado de que este gobierno cuenta

la diferencia está en que el gobierno ha establecido con claridad sus prioridades y hemos tomado una opción garantizar los servicios esenciales

y asumir los ajustes que debemos acometer en el resto de partidas por muy doloroso que nos sea esto último a cada consejera a cada consejero

para facilitar la estabilidad institucional y presupuestaria que la situación demanda sentando las bases de un presupuesto social un presupuesto racional un presupuesto razonado y un presupuesto dispuesto para un futuro próximo mejor

gracias señor lehendakari por sus respuestas pero permítame que le diga que

en esta materia a nuestro juicio no está siendo muy coherente y tampoco muy responsable es cierto que el gobierno del partido popular ha tenido que adoptar medidas difíciles

y la confianza en la economía para salir de la crisis y usted como lehendakari también

medidas difíciles y ajustes porque nadie se puede gastar lo que no se tiene pero ustedes lo están haciendo con un doble lenguaje y a mi juicio con poca responsabilidad por una parte recortan mil doscientos millónes de euros

o hacen declaraciones de este estilo el pnv

o también le podría citar que el pnv anuncia oposición activa a los recortes en todas las instituciones y esto cómo se come con lo que está haciendo usted en este momento a lo mejor es que tiene que hacerlo por responsabilidad

hace falta otra coherencia política hace falta ser más responsables y no hacer distingos entre todo lo bueno que hace usted y todo lo malo que viene de madrid nosotros creemos

que hagan pedagogía y que expliquen que estas dificultades económicas de hoy son inevitables

mire usted suele decir a los demás que tienen que ser responsables y aquí lo ha dicho esta mañana con los presupuestos que usted mismo está haciendo

que a euskadi le vendría muy bien que usted como lehendakari se aplique y aplique en su grupo

predica siempre en política he aplicado lo de arrimar el hombro ha sido mi trayectoria en todas las instituciones en las que he estado

hace falta que haya un hombro al que poder arrimarse que sea sensato coherente

señor basagoiti le respondo en nombre del gobierno del gobierno vasco

el ejercicio de constatación de arrimar el hombro por parte del partido nacionalista vasco en el conjunto de los presupuestos de la arquitectura institucional de la comunidad autónoma del país vasco también del estado español

sé que es el camino más difícil pero es necesario poner los pies en el suelo para poder avanzar incluso para tomar impulso y saltar reitero que nuestro modelo es la puesta por garantizar los servicios esenciales de las políticas públicas sociales presupuesto social y sobre todo vamos a invertir

es lo que se nos está demandando un presupuesto racional y razonado y un presupuesto dispuesto para un futuro próximo mejor con la colaboración espero de todos los grupos

buenos días señor lehendakari señor lehendakari hay quienes pensamos que las competencias fiscales deberían pasar de las juntas generales de los territorios históricos parlamento básicamente con un doble objetivo para alcanzar un sistema fiscal más justo y más progresivo y más igualitario y para evitar de que los ciudadanos vascos paguemos distintos tributos en función del territorio histórico donde residamos creo que más pronto que tarde

más pronto de lo que algunos piensan las competencias fiscales dejarán de estar en las juntas generales de los territorios históricos y pasarán a este parlamento la sensación que tengo

el señor bilbao diputado general de bizkaia afirmó que

tal cosa debería traer como consecuencia que la representación de los territorios en este parlamento fuera proporcional a la población de cada uno de ellos

estas declaraciones por lo tanto yo le pregunto señor lehendakari va el gobierno vasco a reformar la ley electoral para que el voto de los ciudadanos

independientemente del territorio histórico donde este voto se emita una vez que este parlamento asuma las competencias fiscales o incluso aunque no las asuma

señor maneiro he reiterado en muchas ocasiones que el modelo institucional vasco funciona que este modelo nos ha traído hasta aquí

comenzando por la representación de los territorios en este parlamento respaldamos el modelo y el gobierno no tiene previsión alguna de reforma de la ley electoral eskerrik asko

gracias lehendakari nosotros pensamos que el modelo

el modelo foral no funciona bien es claramente mejorable o por resumirlo es un auténtico disparate es decir no tiene ningún tipo de sentido que los ciudadanos vascos paguemos distintos tributos en función del territorio histórico donde residamos esto es se mire por donde se mire y por muy histórico que sea este modelo foral por lo tanto estamos a favor de que las competencias fiscales residan en este parlamento insisto como forma de alcanzar un sistema tributario más justo

los mismos tributos los mismos impuestos independientemente del territorio histórico donde la mejor forma de tener un sistema tributario armonizado y efectivamente también estamos a la par a la vez de la misma forma estamos a favor de reformar la ley electoral para que el voto de los ciudadanos

valga cuatro veces menos que el de un alavés no tiene ningún tipo de sentido y esto hay que modificarlo por lo tanto hay que defender la igualdad y la igualdad del voto vayan mentalizándose porque efectivamente más pronto que tarde las competencias fiscales y la fiscalidad se va a debatir y se va a acordar aquí y esto será bueno para los ciudadanos vascos y nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esto

de reformar la ley electoral para que el voto de los ciudadanos valga exactamente lo mismo tenemos que alcanzar un sistema electoral

nosotros seguiremos insistiendo competencias fiscales de las juntas generales al parlamento vasco y modificación de la ley electoral váyanse ustedes mentalizando porque en breve más pronto que tarde la fiscalidad se debatirá y se acordará en este parlamento y la reforma de la ley electoral

señor maneiro me preguntaba usted por la reforma de la ley electoral y la intención de este gobierno

de la política fiscal en todo caso insisto señor maneiro he dicho que

y sin duda debemos hacerlo he propuesto que lo hagamos además desde una visión integral

y el partido nacionalista vasco el grupo parlamentario nacionalistas vascos el gobierno vasco estamos dispuestos a repensar y a mejorar estamos dispuestos porque tenemos mucho margen de avance pero de avance en nuestro autogobierno señor maneiro lo tenemos que hacer en serio pensando en el futuro pensando en legar algo mejor de lo que hemos recibido he mostrado mi disposición al debate he mostrado la disposición de este gobierno la disposición también del grupo que sustenta este gobierno al debate

es más este gobierno ha mostrado su propósito de abordar en su integridad la definición del futuro del autogobierno vasco y de nuestra arquitectura institucional señor maneiro yo reitero que el actual modelo es una aportación del partido nacionalista vasco y que también en cuanto a lo que es la fiscalidad hay un rango de coordinación tributario reitero que voy a evitar la confrontación territorial

en realidad usted lo ha reconocido quien quiere cambiar la ley electoral por mucho que a mí me preguntara por unas declaraciones de una tercera persona quien quiere cambiar la ley electoral upyd es su partido y no el mío el que propone que la representación de los territorios sea proporcional a la población defiéndalo usted en cada uno de los territorios usted propone esto una y otra vez para españa y justo lo contrario para euskadi quiere llevar la ley electoral vasca a españa y quiere traer la española a euskadi

me reafirmo en que estamos mejor como estamos no sé si otro modelo comporta el grado de cohesión territorial y de cohesión social no sé tampoco si en algún territorial existe internamente tal grado en cualquier caso señor maneiro insisto en lo importante propongo una reflexión de calado general e integral propongo que abramos una comisión de autogobierno en este parlamento que dedique su esfuerzo a mejorar nuestra arquitectura nuestro modelo interna y externamente y a proyectarlo hacia el futuro estoy convencido que con voluntad política podemos mejorar el modelo y avanzar

ni del grupo parlamentario que lo sustenta a cualquier debate sobre esta cuestión en esta cámara eskerrik asko

gracias presidenta señor lehendakari en el debate de investidura usted se comprometió a reordenar y simplificar la estructura del sector público vasco tanto en lo referido al gobierno vasco como en la red de sociedades y organismos públicos con una reducción cifrada en torno al veinte por ciento con posterioridad

usted presentaba en el consejo de gobierno un plan para reducir el entramado público de euskadi un plan que siempre según el señor erkoreka

como el de reducir en un veinticinco por ciento el entramado empresarial público lo cual significaba la eliminación de setenta y nueve sociedades publicas dada la trascendencia política de este anuncio que nos parecía importante el grupo socialista le planteó a usted una pregunta para su respuesta por escrito en torno a diversos aspectos

su impacto económico su repercusión en el empleo público las directrices y criterios de actuación para poner en marcha el plan y los plazos y fases para su desarrollo

a su portavoz como ya lo hiciera por cierto con el destino que se iba a dar a la paga extra de los funcionarios porque donde el señor erkoreka hablaba de una propuesta con objetivos muy concretos

ni de un plan en firme sino tan solo de una reflexión nos decía también que a día de hoy no hay una valoración económica precisa del plan que ahora es reflexión

y en cuanto a los objetivos y criterios generales marcados por el lehendakari para llevar a cabo este proceso de reestructuración y adelgazamiento del sector público esos son sumamente

tampoco nos dice nada sobre el calendario para poner en marcha esa reestructuración del sector público no hay fases concretas y predeterminadas nos dice en su contestación sí la voluntad de abordarlo en los próximos meses la misma indeterminación y falta de concreción sobre este supuesto plan en su día por cierto tan publicitado es la que ha mostrado los consejeros y consejeras de este gobierno al ser preguntado por el grupo socialista y la verdad señor urkullu es que para semejante viaje no hacían falta estas alforjas

sobre las dimensiones que debe tener el sector público vasco no hacía falta anunciar planes inexistentes les bastaba simplemente

de las administraciones públicas que elaboró el gobierno anterior o si quiere usted las actas de la comisión de duplicidades que por iniciativa del grupo socialista se puso en marcha en la pasada legislatura

lo único serio y concreto que se ha propuesto y se ha hecho en este país para racionalizar las sociedades públicas es lo que se ha propuesto y se ha hecho con el anterior gobierno socialista

y no con ningún otro hasta la fecha con el que se ha abierto un debate serio sobre las dimensiones del entramado institucional

un debate que se va a prolongar probablemente en esta legislatura nos parece importante a través de la ponencia parlamentaria que se va a crear y ha sido con el gobierno socialista y no con ningún otro con el que se empezó a desarrollar un trabajo serio y continuado

en los departamentos de agricultura y de industria para reducir sociedades públicas

muchas de las cuales no tenían otra función como es bien sabido que la de perpetuar redes clientelares que el nacionalismo montó desde el poder durante muchos años

su gobierno afortunadamente no parte de cero parte de un trabajo de racionalización administrativa que el gobierno socialista fue poniendo encima de la mesa y en marcha y que es una de esas tantas buenas herencias que han quedado en sus manos y que espero que administren con inteligencia y precisamente porque no parte de cero

señor lehendakari nos avance algo más algo más concreto que lo que nos ha proporcionado sobre sus planes con respecto al futuro del sector público vasco y fíjese que no vamos con posturas maximalistas no le estamos pidiendo que nos ofrezca

un plan acabado y definitivo ya sabemos que eso no es posible somos perfectamente conscientes de que esta es una cuestión lo suficientemente seria como para no improvisar o para anunciar medidas apresuradas que no estén avaladas ni por la reflexión ni por un estudio en profundidad pero sí le pedimos

que nos ofrezca unos criterios con un poco más de enjundia que los que ha ofrecido hasta la fecha sí le podemos pedir y le pedimos que nos ofrezca algunos anticipos de cierta solidez

queremos saber y creo que tenemos derecho a saber cómo quiere ir desarrollando la reestructuración del sector público con qué calendario se propone trabajar para cuándo quiere tener ese proceso terminado qué impacto económico puede tener aunque sea aproximadamente de cuántas sociedades publicas se quiere prescindir

en materia de empleo público sea al menos señor lehendakari tan concreto como lo ha sido su portavoz que ya nos anunció que se tiene intención de suprimir

lo que da una cifra de setenta y nueve si no me equivoco y nos dijo también que esta supresión se produciría además sin tocar el empleo lo anunció el señor erkoreka pero no usted señor urkullu y a lo mejor este es un buen momento nosotros pensamos que sí

lo que su portavoz afirmó en su día nos puede confirmar hoy aquí

puede confirmarnos hoy aquí que el empleo público no se va a resentir por esta reducción puede anticiparnos de alguna manera cómo lo van a conseguir no le estamos interpelando sobre cualquier cosa

le estamos interpelando sobre algo muy suyo le estamos interpelando sobre uno de sus grandes compromisos electorales

como compromiso solemne en el debate de investidura que se celebró en este parlamento y por lo tanto tenemos que suponer que usted lo tiene muy meditado y ha tenido además pensamos

cuenta además con una ventaja añadida y es que según anunció en campaña electoral y con posterioridad a la misma también su gobierno contaba con un programa

no contaba entendemos por eso que no tendrá señor lehendakari mayor inconveniente en explicarnos de verdad lo que quiere hacer y por eso le preguntamos cuáles son
los propósitos del gobierno en relación al sector público vasco muchas gracias eskerrik asko pastor jauna jaurlaritzaren ordezkariak

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok señor pastor no deja de sorprenderme el ejercicio de amnesia permanente que usted y su grupo hacen

no teniendo en cuenta su participación en responsabilidades en gobiernos anteriores y en lo que dicen que ustedes han hecho en el gobierno anterior de donde parte lo que dicen que ustedes han hecho

su interpelación sobre los propósitos del gobierno en relación al sector público recuerdo que su interpelación es cuáles son los propósitos del gobierno en relación al sector público

y lo anuncié en el discurso del debate de investidura

la novena se inició con un proyecto de racionalización planteado en la octava legislatura señor pastor y esa novena legislatura se cerró

más que los acuerdos que usted dice que adoptó el gobierno vasco en relación a dos departamentos pero ni una sola decisión de racionalización del sector público en su conjunto durante los tres años y medio que duró

de esta legislatura vigente presente vamos a tomar decisiones y me explicaré por qué en estos cuatro años empezando por este primer semestre señor pastor

hainbat helburu konprometitu en el propio gobierno vasco contamos con un total de setenta y nueve entidades pero la mayoría de las mismas son sociedades públicas pero tenemos también organismos autónomos entes públicos fundaciones y un consorcio más por lo tanto que las setenta y nueve que usted ha mencionado tenemos que añadir por lo tanto también las entidades participadas dos tercios de ellas propias del gobierno y el tercio restante a través de sociedades de capital riesgo mapa argitzeak esan nahi du badugula lan proposamen bat

en tercer lugar señor pastor y probablemente esto es lo más importante junto con los propósitos el gobierno ha comprometido unos objetivos para la presente legislatura hemos comprometido además de haber reducido la propia estructura del gobierno hemos comprometido reducir en al menos el veinticinco por ciento

y de organismos participados hemos comprometido reducir en al menos un veinte por ciento las estructuras directivas del sector público dependiente del gobierno y hemos comprometido reducir los gastos de funcionamiento también en un veinte por ciento y lo vamos hacer

asumiendo para nosotras y para nosotros mismos lo que proponemos para los demás lo vamos hacer señor pastor además manteniendo unos principios básicos que compartimos y que ya hemos dado a conocer

en las reuniones que he mantenido con los tres diputados generales y con la presidenta de la asociación de municipios vascos de eudel he planteado este objetivo de racionalización

tengo que decir en primer lugar que es compartido dicho objetivo de racionalización y tengo que decir que nuestro compromiso es actuar de una forma concertada

con las diputaciones forales o con los ayuntamientos porque insisto no es solamente algo que afecte al propio gobierno vasco exclusivamente

el planteamiento de la legislatura en su conjunto el segundo principio es el mantenimiento de los servicios esenciales para la ciudadanía vamos a mantener estos servicios estamos proponiendo racionalizar la estructura para mejorar para garantizar

vamos a acometer estas actuaciones precisamente para garantizar los servicios de transporte de promoción económica de educación o cultura que estamos ofreciendo los servicios esenciales a la ciudadana o al ciudadano van a estar garantizados

hau hirugarren printzipioarekin lotzen dut el tercer principio es el mantenimiento del empleo público proponemos reducir la estructura directiva y las gastos de funcionamiento nuestro compromiso es mantener

también el ejercicio durante toda la legislatura para ir acompasándolo a lo que es este compromiso

ehuneko hori es cierto señor pastor que este objetivo de reducción del sector público se había planteado ya con anterioridad lo reconozco pero también

de la que usted habla pero en realidad en la práctica nunca se había acometido con esta naturaleza de afección el actual gobierno vasco ha adquirido el compromiso de hacerlo a lo largo de esta legislatura

con el respaldo de las formaciones políticas de la cámara esperamos lograr aquí este respaldo a los propósitos del gobierno y respondiendo a su interpelación señor pastor

podemos hablar de tres propósitos ya que usted me pregunta por los propósitos

es el económico se trata de reestructurar y se trata de racionalizar también aquí queremos predicar con el ejemplo

no podemos mirar para otro lado y hemos comprometido una reducción de sociedades que llevará aparejada una reducción de altos cargos y de personal de confianza

menos gasto público también lo necesitamos y el tercer propósito en cuanto a los propósitos por los que usted me interpela

durante años la estructura de las sociedades públicas no se ha tocado en tal

es necesario y ahora tenemos la oportunidad de acometer esta tarea estos son los propósitos de acción del gobierno para la presente legislatura señor pastor eskerrik asko

pero el problema de origen es que el portavoz de su gobierno habló de un plan que usted presentó en el gobierno y al que luego cuando yo le pregunte por él usted me contestó que no existía ni como plan ni como propuesta sino a título de reflexión

y espero que los lleve a cabo lo que le hemos dicho también es que hay un trabajo hecho que usted debiera de aprovechar porque también el anterior gobierno redujo su número respecto del anterior

pero no es cierto como usted dice que la anterior legislatura a la del gobierno socialista se empezara nada

elefantiásico que los sucesivos gobiernos del pnv fueron creando en este país y que en la mayor parte de los casos iba destinada a colocar a determinadas personas para darles una satisfacción laboral

con realidades absolutamente esperpénticas que nos vimos obligados o bien a vender las participaciones

se eliminaron estructuras se redujeron cargos directivos se redujo también el gasto que eso proponía porque mire señor urkullu lo de los buenos propósitos está muy bien es aquello de mirarlo muy bien pero

y después haremos lo de mirar es una cualidad inherente a los búhos pero muy poco apreciable de cara a un gobierno yo espero y deseo de verdad sinceramente que esos buenos propósitos que usted me está poniendo encima de la mesa pero que no me ha dado ningún dato concreto más allá de los que ya nos expresó en la sesión de investidura de los que luego quiso concretar el señor erkoreka

el impacto económico siquiera aproximado le he dicho no le he pedido un plan terminado y acabado ya sé que han pasado el tiempo que ha pasado y que tiene que seguir reflexionando pero me gustaría

de concreción al menos para poder tener la garantía de ir evaluando la marcha de ese programa esos buenos propósitos que usted va a poner encima de la mesa porque

le quiero recordar que aquí se han puesto en marcha determinadas medidas por el anterior gobierno que es verdad que a lo mejor tiene usted suerte y puede concertar con todas las instituciones esa reducción y racionalización del entramado institucional vasco pero también le quiero recordar

de las instituciones controladas por su partido para hacer siquiera una reflexión sobre este asunto espero que usted no tenga ese problema afortunadamente nosotros no somos de los que nos dedicamos a poner palos en las ruedas simplemente por meter el dedo en el ojo al adversario y por lo tanto espero que aprenda

de estas declaraciones de principios que todos apreciamos y que son propias de los primeros momentos de una legislatura no se conviertan pasados los meses en una nueva frustración por lo tanto estaremos tremendamente atentos encantados de darle

lo que dice que va ha hacer pero nos gustaría que a la mayor brevedad pudiera tener esta cámara y los parlamentarios que aquí estamos siquiera un esbozo de plan para que podamos saber exactamente de qué empresas hablamos de qué tipos de actuaciones se van a poner en marcha de a quiénes va dirigido

de que no se va a tocar el empleo público existente en esta sociedades publicas muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok propósitos plan propuesta de reflexión reflexión de trabajo

quedarme en los problemas semánticos en todo caso le agradezco y le agradeceré la atención que usted preste a lo que el gobierno vasco vaya ha hacer y le agradecería también en todo caso

representante del partido socialista en los gobiernos de coalición también en lo que es

de la arquitectura institucional de este país y le agradeceré también que supere usted señor pastor la incoherencia en la crítica que hace al gobierno vasco presente

en todo caso los consejeros y consejeras han presentado ya sus líneas generales de actuación en este parlamento en el programa de gobierno que presentaremos

es necesario mejorar la estrategia de gobierno evitar acciones dispersas concentrar las actuaciones le agradecería también que reconociera que

del entramado del sector público dependiente de las propias diputaciones forales de los territorios históricos en cualquier caso es necesario

y es necesario mejorar la gestión de las empresas públicas reducir aquellos gastos que puedan resultar menos productivos liberar recursos para dedicarlos a los servicios esenciales

y le garantizo señor pastor que la determinación del gobierno para actuar

trabajar para concretar se sustenta en unos criterios muy sólidos no lo hacemos de cara a la galería vamos a guiarnos por una política económica tendente a mantener

para este país vamos a desinvertir en proyectos ya consolidados o en aquellos que puedan generar una oportunidad de financiación

que ofrezcan servicios complementarios o similares el gobierno vasco va a tomar las decisiones

caso por caso y lo haremos de la mano de las instituciones concernidas

somos conscientes de que las decisiones de ahorro económico son importantes porque representan un signo inequívoco para la ciudadanía

cuando hablamos de propiedad o de participación pública y tomaremos las decisiones adecuadas para garantizar insisto los servicios públicos a la ciudadanía

vamos a convertir los propósitos por los que usted me interpela en realizaciones y el gobierno actuará el gobierno vasco va a actuar berretsi nahi dut beraz

el principio número veinte del conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de las naciones unidas indica

será mantenida en lo posible en un lugar de detención o prisión situado a una distancia razonable

no acepte los principios internacionales o más aún una resolución concreta

mesedez baxuago jarraitu el hecho de que un estado

una resolución del tribunal de estrasburgo constituye un escándalo político y jurídico

pone de manifiesto su apego a las leyes y las medidas excepcionales contra los presos vascos se vulneran los derechos de los presos y sus familiares se pasa por encima de la normativa internacional de derechos humanos se rehuye de una actitud proactiva humanitaria y conforme a la ley

la transferencia de prisiones no es una prioridad para este gobierno porque somos conscientes de que la transferencia de prisiones y la política penitenciaria forman parte

y del ministerio de interior y por lo tanto nosotros respetamos y no vamos a invadir ese ámbito

la tarea en la que este gobierno está y seguirá empeñado en aprovechar su capacidad de interlocución que la tiene para más haya del ejercicio estricto de las competencias que tiene asignadas en el ámbito penitenciario que por el momento no han podido hacerse efectivas de la negativa rotunda de los gobiernos

correspondiente trabajar discretamente como debe hacerse en este ámbito en favor de una política penitenciaria más flexible y más abierta

los datos de un solo mes nos muestran que las gestiones realizadas no han sido eficaces el recorrido que marcaba el lehendakari con su discreción no se ha mostrado efectivo

de algunos otros responsables políticos de su partido como aitor esteban con declaraciones y reclamaciones que más que ayudar realmente

el reto señor erkoreka es claro contar con los acuerdos y las sinergias necesarias para hacer cambiar la situación utilizar todas y cada una

para evolucionar en materia penitenciaria porque cada día que pasa todos perdemos porque se pierden por el camino

y sus familiares siguen vulnerándose todos y cada uno de los días que pasan todos esos días que nos estamos retrasando

gainditu ahal izateko sobre declaraciones y actos que más que ayudar entorpecen podemos hacer un monográfico de jornada completa entero de actuaciones y declaraciones que

aunque se manifiestan partidarias de conseguir estos objetivos de acercar a los presos en realidad lo que están haciendo es todo lo contrario en nombre de la ética necesaria entiendo yo hay quien necesita formularla

normalak la relación entre vascongadas como solemos decir en navarra que no se utiliza el término comunidad autónoma la relación entre vascongadas

que se ha utilizado con intención política especialmente desde la transición desde mil novecientos setenta y siete porque incluso

no se ponía en duda la relación entre la sociedad vasco navarra y para ello voy a dar una serie de ejemplos que pone en evidencia cómo se ha utilizado de una manera intencionada y parcial

el intento de divorciar de separar las dos sociedades con el objetivo precisamente de que no conformaran una unidad política propia

nahiago duen jotzea caja de burgosera caja de canarias

nafarroa bereizteko esate baterako federaciones deportivas vascas o vasco navarras desagertzen hasi ziren sistematikoki

a pesar de los esfuerzos de diferenciar de distanciar vascongadas de navarra la realidad es terca y haciendo una pequeña prueba superficial hay ciento veintinueve mil entradas en google para el término sociedad vasco navarra cuando solo hay quinientos cuarenta y tres para el término sociedad vasco aragonesa

ninguna que tenga relación con soria y por supuesto ninguna entrada respecto a la sociedad vasco santanderina por ejemplo es decir que la realidad es

tienen no solo una historia tienen un presente eta gure ustez ere tienen que tener un futuro hona etorrita

intergubernamental de carácter permanente con el gobierno vasco urte bete beranduago hain zuzen ere

legez bestekoak el parlamento vasco se compromete a impulsar decididamente todas las iniciativas tendentes a la creación y desarrollo de órganos

gestión y prestación de servicios entre la comunidad foral de navarra y la comunidad autónoma del país vasco previo acuerdo de las instituciones respectivas

a que reconsidere su oposición a la constitución de un órgano común permanente entre euskadi y navarra por entender que su funcionamiento normalizado responde a las demandas ciudadanas mayoritarias de ambas comunidades unidas por lazos históricos culturales económicos

esan zutenean que tenían intención de promover la creación de un institucional común para los cuatro territorios beste behin ere mutu

diozunarekin dice usted en la justificación de su interpelación señora mintegi que la relación que se establezca

tiene una enorme importancia en la estructuración económica y social de euskal herria evidente

desea usted conocer la postura del gobierno y más concretamente del lehendakari sobre las relaciones y le digo

la postura es favorable evidente siempre lo ha sido argi daukagu mintegi andrea bi administrazio juridikoen artean harreman horiek

expuesta comparto el objetivo de impulsar y desarrollar las relaciones con la comunidad foral de navarra y comparto la necesidad de hacerlo en todos los ámbitos

en el pasado es cierto y creo que podemos generalizar porque la considero importante en todos los ámbitos posibles me pregunta usted sobre la postura del nuevo gobierno vasco sobre las relaciones entre ambos gobiernos

es favorable y es constructiva somos conscientes de que también en este terreno se nos abre una nueva oportunidad conocemos bien

vivimos un nuevo clima político e institucional y nuestra postura la del gobierno vasco es poner este clima al servicio del impulso y el desarrollo de estas relaciones no obstante sí le quiero decir y adelantar que lo vamos a hacer

estamos promulgando la concertación como herramienta de respuesta a las demandas y necesidades sociales y este mismo espíritu de concertación es lo que queremos aplicar también en este caso

diálogo para la concertación especialmente desde las instituciones públicas esta es nuestra voluntad eso sí

de una de las dos partes necesarias para avanzar en el diálogo y el acuerdo herritarren kezkak ez dira nire ustez oso desberdinak gure bi erkidegoetan

vamos a facilitar por lo tanto en la medida de lo posible desde el gobierno vasco las relaciones con el gobierno de navarra y lo vamos a hacer con respeto pero también con determinación pero sobre todo con convicción plena

estas relaciones de mutuo acuerdo porque sabemos que son de mutua conveniencia

tengo que reconocer señorías que la voluntad del gobierno vasco en este punto siempre ha sido positiva siempre hemos estado abiertos a la colaboración y también ahora lo estamos

signos positivos creo conocer bien personalmente la realidad política e institucional de navarra la conozco y la respeto desde esta doble premisa creo que podemos avanzar no me cabe duda

es extensa y no me cabe duda de que la relación de razones

extensa todavía tenemos mucho camino que recorrer juntos en los ámbitos de infraestructuras de los servicios públicos

y también en los ámbitos de superación de años de terrorismo y de construcción de una nueva convivencia normalizada políticamente también

y nuestro gobierno tiene voluntad y contamos con una experiencia que nos puede resultar de gran utilidad en este momento en este nuevo tiempo

bide beretik eta instituzioen arteko errespetutik beraz soy optimista insisto no partimos de cero

en la primera intervención hacía referencia a algunos de los antecedentes que han podido existir en mil novecientos noventa y cinco por ejemplo usted

ese sería mi deseo también como lehendakari del gobierno vasco y un año después decía usted

se aprobó el acuerdo de cooperación entre la comunidad autónoma del país vasco y la comunidad foral de navarra un acuerdo que establecía un marco permanente de cooperación

de encuentro como usted ha mencionado también ahora en su segunda intervención un acuerdo que se consiguió aunando las voluntades de las dos comunidades

antecedente un antecedente por el que quiero trabajar también como lehendakari más allá de lo que sea el trabajo en su conjunto del gobierno vasco y de lo que afecte

por lo tanto tenemos un buen antecedente para seguir trabajando el antecedente del año mil novecientos noventa y seis o otras conversaciones a las que usted ha mencionado también en su primera intervención muy positivo para nosotros y el antecedente del año mil novecientos noventa y seis señora mintegi permítame que se lo diga también no sé si tan positivo

y se lo digo porque entonces ustedes lucharon y batallaron y se opusieron a esta propuesta se posicionaron en contra y votaron en contra y en su rabiosa oposición en aquel momento votó en contra coincidieron con upn una coincidencia que se clarifica por sí misma señora votaron en contra de una oportunidad histórica en aquel momento también para la izquierda abertzale para la herri batasuna

se manifestaron contra este órgano permanente de encuentro al que usted ha hecho referencia entre las dos administraciones jurídicas de hego euskal herria tal y como usted la denomina hoy y le recuerdo la portavoz

con estas palabras no tiene derecho a meter a este pueblo en un marco que está dentro de la constitución y hoy leyendo la formulación de su interpelación

intuyo que lo que antes no valía ahora sí puede valer intuyo que quizás sean favorables ahora a desarrollar este marco y si esta intuición es acertada

nunca es tarde dice el refrán si la dicha es buena dena den

lehendakari como usted bien sabe los ingresos fiscales son el elemento clave para la intervención pública y para las políticas presupuestarias

de la riqueza en el marco de una política europea que es insolidaria y que nos castiga a las economías con mayor dificultad a la contención del gasto con unos objetivos de déficit antisociales y también al pago

especulativos hoy esta política que día a día nos lleva a una mayor recesión económica y con ella a una destrucción del tejido productivo y de las políticas públicas necesita respuestas lehendakari o la política rompe esta armonía entre los especuladores y las políticas conservadoras o se da a la sociedad

y que si hoy tenemos un ciclo bajo mañana tendremos un ciclo alto

por la generación de riqueza y por como se reparte y cada vez se reparte peor cada vez se reparte más injustamente e incluso los acuerdos y objetivos

resultan falsos hipócritas y se aplican como se quieren sin ningún tipo de rigor y de sensibilidad social la evolución del déficit que mucho tiene que ver en la capacidad de gasto de los gobiernos así lo demuestra mientras el gobierno de españa fijó en un seis coma tres por ciento el déficit para dos mil doce ahora del seis coma siete por ciento cuando en realidad y con la factura

de la banca el déficit real será del diez coma dos otro tanto ocurre con las comunidades autónomas donde sobre el objetivo

y desde el cumplimiento en euskadi de ese objetivo el gobierno rajoy

hace una media de todas las comunidades autónomas y nos habla del uno coma setenta y tres como si estuviéramos cerca de haber cubierto esos objetivos cuando algunas comunidades autónomas como bien sabemos todos gobernadas por el partido popular han superado el tres por ciento de déficit señor urkullu

todo lo que se pueda hacer desde las instituciones de los diferentes ámbitos políticos es lo único y más cercano que la ciudadanía tiene para recibir atención sanitaria educación atención social

ayudas a la economía productiva y para que los presupuestos atiendan a los dramas y a las necesidades ciudadanas todo lo que se haga debe tener el máximo rigor y la máxima fiabilidad para la ciudadanía y también para la acción política

usted reclama apoyos políticos para que se le ayude a su gobierno a disponer de unos presupuestos es razonable que así lo haga es igual de razonable que la ciudadanía y sus representantes los grupos políticos de esta cámara

al mismo tiempo una invitación al esfuerzo compartido y una enorme ceremonia de confusión sobre la fiabilidad de los recursos disponibles

esos presupuestos usted quiere socios para hacer recortes por importe

y a la vez nos dice que se puede hacer un recálculo de ingresos y mediante aumento reducir

de esos recortes a este respecto quiero señalarle que ya en el consejo vasco de finanzas donde se fijó los ingresos previstos en octubre del dos mil doce

haciendo pero que se abstendría porque esta era tarea del nuevo gobierno entonces ustedes no quisieron mover ficha sin embargo y ojo

había transcurrido todo el año dos mil doce cuando ustedes ya estaban en el gobierno en enero de este año dos mil trece teniendo datos reales más actualizados sobre la recaudación de dos mil doce y sobre las tendencias de recaudación para dos mil trece de repente nos someten a un debate

de los ingresos la pregunta sería cuándo han cambiado ustedes el guión por qué ustedes en ese momento empiezan a cambiar la contestación está a la vista cuando llegan al gobierno cuando tienen la posibilidad de hacer ustedes esos cálculos directamente o cuando va en beneficio

es cuando ustedes señalan esa posibilidad de recálculo que sin ninguna duda estaba antes en las posibilidades de valoración

pero además una vez que sacan ustedes este debate público

vuelven a cambiar el guión cuando la diputación de álava gobernada por el partido popular y la diputación de gipuzkoa gobernada por bildu

lo paran argumentando que lo hacen para no perjudicar los apoyos políticos al presupuesto vasco y que prefieren dejar las cosas como están y aquí surge también

se conforma con menos y si en vez de apostar por menos recortes apuesta por más y si además hace la argumentación de que no quiere entrar en confrontación con la diputación foral de álava y con la de gipuzkoa

del partido popular y de bildu que estén de acuerdo con esos ingresos y por lo tanto que estén de acuerdo con lo que acompaña a esos ingresos y que

con el apoyo presupuestario pero esta no es la única duda porque asumirá usted que de las manifestaciones que han hecho a lo largo de este tiempo el señor bilbao el señor rementeria el señor

erkoreka lo que hoy queda salvo que todos hayan dicho cosas inexactas o hayan mentido es que se podía haber hecho un recálculo pero que por razones al margen de los ingresos posibles conviene aparcarlos señor urkullu los socialistas no podemos dejar pasar por alto

que no son necesarios porque ustedes podrían evitarlos con más recursos señor

ni crea confianza ni acerca a partidos diferentes ni da estabilidad a los presupuestos ni es respetuosa con la ciudadanía señor

con los ingresos para quizás sacarlos más adelante y para envolverse entonces artificialmente en un manto de buen gestor deje

como está el estado de los recursos en estos momentos en el país vasco le escucho eskerrik asko prieto jauna jarraian

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señoría decirle que el gobierno vasco y usted tiene información

tiene ya una previsión de ingresos y la previsión de ingresos es la que deriva del consejo vasco de finanzas de octubre del dos mil doce donde se hace una previsión de aportaciones y de recaudación para el dos mil trece fijada esa previsión

es con esos ingresos con los que se efectúan los trabajos y la confección del presupuesto de este año tiene que tener en cuenta también

en el marco económico presupuestario deobjetivo de déficit que conllevan un menor endeudamiento este año igualmente sabe su señoría que existe unos menores ingresos derivados

que no tienen en este año el volumen que han tenido en años anteriores todo eso y lo sabe usted directamente señoría obedece a un importe aproximado de mil doscientos millónes de euros

y el juego de la deuda y los ingresos derivados de activos financieros de venta de operaciones financieras

plantea usted al gobierno sobre la fiabilidad de los ingresos pues esos son los ingresos

determinados hablaba usted del recálculo de los ingresos del que se ha hablado en enero del dos mil trece mire en diciembre del dos mil trece entran en vigor dos normas forales

y en gipuzkoa que tienen su origen y su sustrato en la ley de acompañamiento de los presupuestos del año dos mil trece del presupuesto del estado en virtud del cual

una normativa de actualización de valores de inmovilizado de empresas individuales o societarias que es trasladada también

tributarias de estos dos territorios a finales del mes de diciembre a inicios del mes de febrero la diputación foral de gipuzkoa efectúa la misma actuación normativa y aprueba un decreto foral normativo de esas mismas características con efectos a diciembre del dos mil once

bien sea en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto sobre las sociedades de empresarios de una u otra naturaleza es a treinta y uno de diciembre de manera que

devengarán la liquidación y el ingreso de la cuota correspondiente

y a finales de julio en el caso de las empresas de naturaleza societaria las normas están vigentes cómo surgen esas normas sustentadas en una actualización de balances que se producen en el estado en qué periodo en el periodo que va

de aprobación de las previsiones en el consejo vasco de finanzas al periodo de elaboración de los presupuestos del gobierno vasco para el dos mil trece

aportaciones fijadas y nueva normativa no es que si hubiera podido estimar esa previsión

una normativa objetivada que regulara esta cuestión en ese momento sino que surge con posterioridad nosotros como gobierno presentamos una propuesta a los otros miembros del consejo vasco de finanzas a las tres diputaciones y existe una disparidad de opiniones entre la propuesta que les hacemos

para el conjunto del sistema que entendíamos que podía rondar en esta materia unos trescientos millónes de euros y dos diputaciones forales la de álava y la de gipuzkoa

entienden que a pesar de que incluso ese mismo día el mismo día que nos reunimos en gipuzkoa entra en vigor

ingresos y liquidaciones entre junio y julio del dos mil trece no está de acuerdo en una estimación que nosotros hacemos y en ese momento consideramos

previstas en octubre del dos mil doce no era conveniente

el portavoz del grupo al que pertenece su señoría de que esto podía originar unas consecuencias en el parlamento

una posible enmienda a la totalidad a los ingresos una enmienda de los ingresos tiene una naturaleza de totalidad y por lo tanto podía poner en peligro la tramitación ordinaria

del dos mil trece el lehendakari y yo analizamos esta cuestión

del debate de investidura de buscar acuerdos en órganos institucionales y este es el órgano institucional del que pende el gobierno

y la labor legislativa es dirigida por ustedes aunque puede ser promovida por el gobierno es por lo que entendemos

a esas manifestaciones públicas y habiendo discrepancia no queríamos adoptar una decisión en un órgano

pero en un órgano de control y facultad legislativa como la cámara que ya habían hecho públicamente diferentes portavoces parlamentarios que no se iba a estimar nosotros creíamos que estaba fundamentado pero había otros

portavoces conforman la mayoría en esta cámara entendimos que no era lo adecuado en ese momento en ese sentido nosotros estimamos que el presupuesto del dos mil trece

y esa evolución conllevará que en la reunión del consejo vasco de finanzas que se celebrará a mediados de octubre del dos mil trece

una inyección al sistema ayuntamientos diputaciones gobierno y nos ayudará fundamentalmente al gobierno porque somos

que tenemos más gasto para poder ir cubriendo carencias que el proyecto de presupuestos que como sus señorías saben por información directa que tienen tiene el presupuesto por esos menores

tenemos previstos presupuestar en el lado de los ingresos evidentemente para este gobierno era mucho mejor presentar un presupuesto reducido o disminuido

pero ese esfuerzo lo hemos hecho en aras a que

lo presentamos pero su tramitación y su plasmación en ley lo tienen que aprobar sus señorías en esta cámara y ese es el contenido y la finalidad

realizado esta actuación en el consejo vasco de finanzas retirando la propuesta que a las tres diputaciones fundadamente presentamos

las referencias que usted hace a la diputación foral de gipuzkoa y a la diputación foral de álava

le reitero no hay ningún acuerdo raro ni opaco con ninguna diputación las diputaciones hicieron su valoración su estimación

ya he manifestado y es público el criterio que mantuvieron los diputados generales al respecto y por lo tanto no hay ninguna vinculación con la posición que la diputación foral de gipuzkoa o la diputación foral de álava puedan tener y por lo tanto con los grupos parlamentarios con los que ellos tienen relación bien sea con el partido popular o con euskal herria bildu no están vinculadas unas cosas con otras ni tiene este gobierno

euskal herria bildu sobre esta cuestión se lo he dicho que fue una decisión que meditamos en el gobierno y que el lehendakari entiende que el acuerdo lo que tenemos que conseguirlo es en esta cámara porque esta es la cámara

nos sometimos a la consideración que ustedes estimen oportunos en la tramitación del proyecto de ley sabe

este gobierno tiene el canal abierto permanentemente en relación a la elaboración del proyecto de ley de presupuestos tanto para hablar de ingresos como para hablar de gastos todavía faltan unos días para la aprobación en consejo de gobierno el doce de marzo y tendremos oportunidad

añadible de trascendencia respecto a la información directa que ustedes conocen lo tendremos en consideración y se lo comunicaremos este es el correlato de hecho que yo

base a la interpelación de su señoría quería manifestar esta mañana nada más y muchas gracias eskerrik asko

miren la que han liado ustedes en enero

proporcionar las nuevas figuras tributarias y a la luz de ello nos planteamos recalcular en febrero para ampliarla y no para disminuirla

las previsiones de ingresos en función de unas reformas que tuvieron lugar después del cálculo que se hizo en octubre del dos mil doce

alrededor de doscientos millónes de euros más de lo previsto gracias a los cambios normativos realizados en materia fiscal

normativa permite estimar un mayor número de ingresos fiscales para el año dos mil trece las modificaciones normativas afectan a la actualización de balances de las empresas

una recaudación extra de unos ciento cincuenta millónes de euros la cantidad restante hasta los doscientos millónes del recargo sobre la producción de energía eléctrica bilbao rechaza que su propuesta de que el consejo vasco de finanzas revise al alza

permita elevar el techo de gasto del gobierno vasco en los presupuestos de este año y que se trate de una maniobra contable y defiende que su iniciativa es consecuencia de una previsión rigurosa y real a la luz de los doscientos millónes se estima que se va a rascar con la nueva figura impositiva el diputado general de bizkaia aboga por no desdeñar la opción de reformular los ingresos y dice que lo va a trasladar al consejo vasco de finanzas de febrero

de aparcar la revisión al alza de estos ingresos y además

y ya se lo contaré bien posteriormente el señor gatzagaetxebarria

dice que de haberse aprobado el recálculo lakua podría haber contado con doscientos millónes más

de cien millónes y así se elevarían las estimaciones de octubre que se hicieron en el consejo vasco de finanzas declaraciones a diestro y siniestro de

del gobierno vasco de sus consejeros diciendo que se puede revisar

una perla del señor bilbao un remate en el que dice los que se quejan de recortes no quieren el ajuste critica bilbao el único dirigente peneuvista que se ha desmarcado

porque dice que se puede tener más ingresos para hacer los presupuestos pero que no

mire yo le he interpelado a usted señor urkullu

no porque no me valgan las explicaciones de cualquier miembro de su gobierno le interpelado a usted porque ustedes han creado una ceremonia de confusión

cuáles son los ingresos de verdad con los que puede contar el presupuesto vasco ese es el gran problema y en esa ceremonia de la confusión han participado sus consejeros

una palabra fiable alguien que estuviera por encima de todos ellos alguien que pusiera orden y concierto no el señor gatzagaetxebarria no porque el señor gatzagaetxebarria es parte de la ceremonia de la confusión porque en sus declaraciones también abogó porque hubiera más dinero para hacer los presupuestos

a dar la cara como hacía el anterior lehendakari cuando se le interpelaba que daba la cara siempre porque hay que dar la cara cuando hay problemas importantes en este país y saber cuáles son los ingresos para hacer los presupuestos es un problema demasiado grave como para que usted se quiera escapar de aquí y para que luego como ya

reflejado yo el señor gatzagaetxebarria más adelante quizás puedan venir

unos excelentes gestores a consecuencia de impedir

con los cálculos reales el señor gatzagaetxebarria decía los unos y los otros al referirse al consejo vasco de finanzas los unos serían el partido nacionalista vasco que

bildu y el partido popular que no lo querían y hablaba de los unos y los otros y de la armonía

para hacer el presupuesto y que por lo tanto había que hacer el ingreso

mire usted el presupuesto no es el presupuesto de seis señores del país vasco no es el presupuesto de los señores no es el presupuesto de los unos y los otros es el presupuesto de los vascos de dos millónes doscientos mil ciudadanos de este país que tienen un consejo vasco de finanzas

hoy alteradillo esta mañana tranquilícese le pido

que tiene información directa y lleva una trayectoria institucional larga pero bueno es habitual

este tipo de debates bien hombre

no debate en este momento con usted pero hombre yo le puedo recordar a usted no es cuestión de tirar de hemeroteca

al anterior lehendakari y delegaba en otros miembros del gobierno

y no quiero profundizar más en esa cuestión yo creo que lo importante es el fondo dejando

y pues luego el repertorio de leer de hemeroteca parece que no había contenido ya más para llenar cinco minutos entonces ha tenido que coger de hemeroteca y decir lo que decían otros porque entonces igual

en el fondo pero ya le he dicho en mi primera intervención

rara no no es que en diciembre de dos mil doce

publicado en el boletín oficial de veintiocho de diciembre en álava el decreto foral

también publicado en el boletín del territorio de veintiocho de diciembre gipuzkoa lo hace a través

de cinco de febrero que lo publica dos días más tarde el estado lo tiene esto regulado y presupuestado en la ley

de acompañamiento a los presupuestos en navarra lo tiene en la ley

en el caso del país vasco las normas están aprobadas hay un dato fundado razonado entre el veintidós de octubre y la reunión del consejo vasco de finanzas de febrero del dos mil trece ya le he dicho anteriormente no lo voy a reiterar

entendíamos que teniendo mayoría en un órgano institucional importante como el consejo de finanzas no hemos querido

a pesar de que ha sido muy doloroso y creemos que era mejor no solo para el gobierno para los ciudadanos el que la disminución del gasto del gobierno sea lo menos posible no es lo mismo mil doscientos millónes que mil millónes

que había en la mayoría de los grupos de la cámara

y le reitero que el lehendakari lo que entendió que era oportuno era cumplir su voluntad y llegar a un acuerdo en este órgano y nosotros pues tenemos que concitar

los presupuestos del dos mil trece con los diferentes grupos que hay en la cámara ese es el alcance la finalidad y el contenido de esta actuación en la materia yo no le puedo decir

que esto es una cuestión que afecta a los ciudadanos y lo están decidiendo no no unas personas y no sé qué órgano no es que el consejo vasco de finanzas está representado por

de haber sido los partidos mayoritarios en cada uno de los territorios y nosotros representamos a la mayoría minoritaria de la cámara que fue

esta cámara es soberana en la aprobación de los presupuestos y entendíamos que una discrepancia de esa

ingresos que puede conllevar a la impugnación de los ingresos

diferentes grupos parlamentarios con diferentes opiniones en cuanto al contenido del presupuesto pero en la coincidencia sobre una estimación de ingresos no correcta puede dar una confluencia en la votación o en la fijación de la posición política de la cámara que nos lleve a un rechazo de los presupuestos

conveniente ni oportuno ni era prudente retiramos la propuesta que dos días antes habíamos planteado a los diputados generales lo que vamos a trabajar en el gobierno es por tener unos presupuestos en el dos mil trece porque creemos que el país es importante que los tenga funcionar con una prórroga es funcionar con una distorsión importante en la gestión porque tenemos un importe de gastos que son los créditos finales del dos mil doce

y los determinados por las reglas del marco económico financiero de déficit y deuda por eso ante esa fricción o distorsión que pueda hacer una prórroga apostamos seriamente porque tengamos presupuestos